desde luego es necesario abordar una evaluación continua de lo que estamos haciendo para desarrollar nuevas políticas en el ámbito o corregir las que estamos desarrollando establecer en definitiva mecanismos de evaluación que posibiliten tanto el aprendizaje de políticas el policy learning

así como la mejora y adecuación de las políticas que ya estamos desarrollando

en primer lugar la de la propia red vasca de ciencia tecnología e innovación y por otra parte la de los programas públicos de innovación siempre referidos al departamento de

a manera de conclusión diría que la introducción desde luego de un sistema eficaz de monitorización y evaluación del sistema de innovación va a repercutir directamente en la eficacia del sistema

el desarrollo económico la creación de riqueza y el bienestar de la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko

egingo dugu insisto señorías en que el gobierno ha puesto el foco en lo importante por encima de disquisiciones en función de lo publicado hasta ahora lo importante es la necesidad

las pequeñas y medianas empresas las personas autónomas y los profesionales comprometí en este parlamento y leo literalmente crear un fondo de financiación

este fondo lo aprobará el consejo de gobierno este próximo martes va a ser un fondo con dotación suficiente y con todas las garantías

un compromiso con las entidades financieras y con las sociedades de garantía recíproca es el primer paso el primero y se lo digo conscientemente

no hablaría de que haya quedado sin efecto ningún plan tal y como se ha comunicado

conocen de primera mano el planteamiento del gobierno vasco

insisto el del gobierno vasco no descartamos nada y no descartamos a nadie lo importante es comenzar y avanzar

una necesidad que nos plantea la economía real responder a la necesidad de financiación

las entidades de previsión social voluntaria si así lo deciden borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakundeek beraien erabakiak hartuko dituzte

sailburu legebiltzarkideok egun on denoi señor consejero hay cosas que nos sorprenden y cosas que inquietan

nos sorprende y nos inquieta que este gobierno haya decidido paralizar la ejecución de un proyecto avalado científicamente nos sorprende y nos inquieta que este gobierno prescinda de una financiación ventajosa para un proyecto de futuro

que este gobierno pueda frenar un cambio histórico de apuesta por la investigación y la innovación

que este gobierno prescinda de las bases para salir de la crisis con un modelo que se aleje del que ha arrastrado a europa a la crisis

deje en el aire un proyecto impulsado hace dos legislaturas

con independencia del color del partido que las haya dirigido nos sorprende y nos inquieta que un proyecto de investigación prescinda del criterio de los investigadores

por esta decisión de paralizar biocruces además de perder el tren de la investigación biosanitaria

una penalización por esta decisión por ello le preguntamos señor consejero de salud cuál es la valoración del gobierno en relación al coste que tendrá para las arcas públicas del país vasco la no ejecución en plazo y por tanto

por el proyecto de biocruces eskerrik asko

porque me parece que refleja bien la verdadera importancia que la pasada legislatura

y la utilización interesada y demagógica que se pretende hacer ahora del mismo para entender mejor lo ocurrido me van a permitir que haga un poquito de historia

y que además esta financiación estaba ligada al compromiso de disposición

en el hospital universitario de cruces lo que no dice usted es que el compromiso respecto a la ejecución del edificio establecía la finalización del mismo

resultaría ahora mismo absolutamente imposible así

para permitir la construcción del edificio de investigación en la parcela del hospital universitario de cruces posteriormente

dado que el proyecto básico contenía modificaciones respecto a las características iniciales previstas

viéndose también obligado a variar el plan especial antes mencionado en concreto el veintisiete de enero del dos mil diez el técnico municipal de planificación urbanística valoró el informe al respecto

la presentación de una nueva documentación para la que le concedió un plazo de quince días el interés demostrado en la anterior legislatura es tal que esta documentación se presentó

del dos mil doce o sea veintiséis meses después del requerimiento menos mal que se trataba de un proyecto estratégico y que debía estar en marcha en el dos mil quince dicho esto

en la actual coyuntura económica y para este departamento de salud los ajustes indispensables en el

aconsejan volver a retrasar este edificio y así lo hemos planteado sabe usted tan bien como yo que compartimos la importancia del proyecto biocruces pero este proyecto es mucho más que un edificio nuevo que sin lugar a dudas puede esperar

entendemos que las condiciones de devolución del crédito pueden ser favorables dado que se trata de una devolución voluntaria no sujeta al incumplimiento de ningún plazo

no me ha contestado lo que le he preguntado hacerme la historia de cómo se ha gestado el instituto de biocruces

cuánto trabajó la legislatura del señor ibarretxe para conseguir cero en el desarrollo del instituto biocruces de modo que en la anterior legislatura

pero la pregunta de hoy no es cómo se gestó biocruces ni hasta dónde hemos llegado mire usted aquí tengo el acuerdo del ministerio de educación y ciencia

que dice que el instituto tiene que estar finalizado para el dos mil quince y usted

que el gobierno vasco no tiene dinero para hacer el biocruces si no pone el dinero el gobierno vasco el gobierno vasco no pone un duro para biocruces

y ahora diga usted que ha hecho los cálculos de cuánto nos va a costar devolver ese dinero al ministerio de educación y ciencia porque si retrasa usted un año el inicio de la construcción no va a cumplir el compromiso de finalizar en el dos mil quince

y eso es por lo que le preguntamos usted tiene que saber cuánto dinero es lo que realmente va a costar su decisión al gobierno vasco y precisamente habría que decir lo que dice todo el mundo con la que está cayendo usted cree que el gobierno vasco se puede permitir el lujo

un instituto de investigación que tiene

de la crisis para este país y encima que tenga un coste económico por qué

y que el gobierno vasco no lo puede construir y que tiene que retrasar esa es una decisión que no entendemos porque ni tiene coste para el gobierno la decisión de construir
y sí tiene coste la decisión de retrasar muchas gracias eskerrik asko roncal andrea jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

no engañamos a nadie es más no paramos la investigación del instituto biocruces vamos a apoyar

la investigación de biocruces no es un edificio que puede estar acabado en el dos mil quince en el dos mil dieciséis

le voy a reseñar que el quince de octubre de dos mil doce el lunes anterior a las elecciones autonómicas fue cuando el director general de osakidetza

se está haciendo especial énfasis en trasladar una idea

y falsa para euskadi es la de presentar a eta como necesaria para responder a un supuesto conflicto y a las víctimas presentarlas como meras consecuencias de no haber hecho caso a la banda es decir están intentando dar razones

como ayer oímos en esta cámara el objetivo del mundo de eta

es blanquear su historia para justificar su propia actuación

es la organización de foros en los que

o se utilizan a equiparadores de la realidad vasca con dictaduras con guerras

usted señor lehendakari antes de estar en el cargo institucional que ahora ocupa ha participado en alguna de esas mesas blanqueadoras por eso le quería preguntar en este pleno que qué le parecen los foros del mundo de eta

estos días qué valoración realiza usted sobre los foros que se realizan en euskadi para tratar de construir un relato legitimador

lo ha querido ligar con lo que ayer fue un motivo de debate con el tema de las consecuencias del conflicto

y ha hecho referencia a lo que en virtud de unas responsabilidades anteriores a las que ahora como lehendakari tengo yo haya podido hacer o no hacer en todo caso me pregunta qué valoración realizo de un foro que trate de legitimar a eta tiene usted por lo tanto información señor basagoiti directa

y con los que he tenido también relación por lo tanto sabe usted que ni he participado

como tal foro trate de construir un relato legitimador de eta lo sabe usted ni he participado ni voy a participar

porque entiendo que para acabar bien

de la historia del país vasco hay que ir un poco más lejos de la frase de decir eta no

o convivencia creemos que es imprescindible que se traslade a la sociedad con mayor énfasis lo y lo injustificable de lo que ha hecho eta para poder vivir en paz

que seamos todos exigentes empezando por usted y su gobierno con aquellos que lejos de reconocer su culpa están dando cobertura

en foros o en plenos como este entendemos que hay que poner en su sitio a batasuna a bildu

activos a favor de la libertad a favor de la justicia a favor de la sociedad vasca

ha obligado a que la banda haya tenido que cambiar de camino si se deja que se blanquee sin más a eta con foros verificadores mediadores reconciliadores y demás si se permite que la aberración de que se prestigie o que se exculpe la acción de eta el virus ese virus seguirá latente en la sociedad vasca

ni yo ni ningún demócrata mire yo creo que hay una nueva etapa en la sociedad vasca sin el dramatismo en los últimos decenios

hoy mismo salimos más tranquilos de nuestras casas quienes no lo hemos hecho durante muchos años y no por un favor de nadie sino porque

y les hemos ganado en parte pero creo que nunca podremos olvidar la receta que nos ha traído hasta aquí que ha sido ley y exigencia democrática un suelo ético sólido con cimientos democráticos son la mejor y única vacuna

lehendakari jauna es que aplique esa receta sin descanso por el bien de euskadi eskerrik asko

a eta estoy seguro de que tampoco este parlamento no ya solo como lehendakari ni como gobierno tampoco el parlamento no lo vamos a hacer

y se va a decidir aquí no lo va a decidir ningún foro más que este foro que el propio parlamento vasco

nadie ningún otro foro que no sea este el del parlamento vasco y lo que le propongo a usted también es que lo hagamos que lo hagamos

a otros foros pensando en que otros foros son sustitutivos de la voluntad de la sociedad vasca aquí representada

a lo que este parlamento tiene que dilucidar y tiene que decidir y le propongo que no nos entretengamos por lo tanto mirando a otros foros

a que en mi andadura también como parlamentario observe lo que es el compromiso con los derechos humanos que he manifestado una y otra vez y le propongo por lo tanto este foro el nuestro el del parlamento vasco y se lo voy a repetir cada vez que tenga ocasión

el gran reto de este país este es el reto de nuestra generación porque creo sinceramente que nuestra responsabilidad es edificar una nueva euskadi en paz y en convivencia la euskadi que no hemos conocido

la euskadi que nuestros padres y abuelos y nosotros queremos para nuestros hijos el foro insisto está aquí estamos aquí todos representados todos y todas aquí podemos

lehendakari ustedes han presentado un proyecto de presupuestos plagado de recortes y de ajustes ustedes lo que han venido a decir durante los últimos meses y durante las últimas semanas es que esto es lo que hay y que este proyecto de presupuestos es consecuencia

en las que nos encontramos yo le quiero preguntar señor lehendakari qué va a hacer usted qué va a hacer su gobierno además de lamentarse de la situación económica en la que nos encontramos qué va a hacer para sacar a euskadi

qué medidas va a impulsar para incentivar la actividad económica y para crear empleo qué medidas políticas económicas y fiscales en definitiva va a impulsar usted para evitar futuros recortes presupuestarios

entiendo que un gobierno y un lehendakari no pueden limitarse a cuadrar las cuentas deben tomar decisiones políticas económicas y fiscales

a los ciudadanos se puede salir de la crisis pero esas medidas económicas y fiscales son absolutamente indispensables y yo le pregunto por ellas gracias

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok señor maneiro prefiero insistir

en lo que dije el martes en la presentación del presupuesto del gobierno para el presente ejercicio y lo reitero insisto nuevamente el gobierno vasco en dos mil trece hubiera gobernado quien hubiera gobernado hubiera gobernado quien hubiera gobernado tendría siempre nueve mil trescientos dieciséis millónes de euros de presupuesto hubiera gobernado quien

ni más ni menos este es un ejercicio de puro realismo

tenemos unos ingresos marcados por el consejo vasco de finanzas del mes de octubre pasado y esta es una realidad derivada de la caída económica aun así

y tenemos una autorización del déficit del cero coma siete por ciento del pib y esto es ley esto es ley señor maneiro

esta es la realidad es cierto que podremos contar con nuevos ingresos a lo largo del año pero no vamos a caer en el cuento de la lechera

la decisión política que hemos adoptado señor maneiro es que ha sido precisamente primar lo esencial lo que hemos querido subrayar primar los servicios esenciales de sanidad educación y protección social la prioridad de este gobierno

son las personas muy especialmente muy especialmente este año los servicios esenciales a las personas y más especialmente todavía las personas más necesitadas el setenta y tres coma nueve por ciento de nuestro presupuesto está destinado a los servicios públicos esenciales

y en esta respuesta me quedo señor maneiro eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

lehendakari necesitamos un gobierno y un lehendakari más ambiciosos que no solamente nos traslade malas noticias y nos explique lo mal que está todo

para salir de la situación en la que nos encontramos vamos a ver como asunto previo estrecheces presupuestarias en las que nos encontramos los limitados recursos que hoy tenemos son consecuencia directa directísima de lo que en el pasado no se hizo de lo que en el pasado no se quiso hacer por parte de su partido político también y por parte

las instituciones en euskadi se tenían que haber impulsado una serie de reformas y voluntariamente se decidió que no se iban a impulsar esas reformas

pero qué es lo que no se hizo y por qué no se hizo antes no se impulsó la reforma fiscal necesaria para tener más recursos y para tener un sistema fiscal más justo no se racionalizó convenientemente el sector público para reducir el número de empresas entes fundaciones absolutamente

no se ha querido reformar el entramado institucional vasco no se ha querido reformar

y no se ha querido luchar más y mejor contra el fraude fiscal esto son decisiones políticas que se tomaron en el pasado como consecuencia de las mismas estamos en la situación en la que nos encontramos pero un gobierno no puede únicamente limitarse a cuadrar cuentas no puede limitarse a decir lo mal que está la situación estas reformas que eran indispensables antes son también fundamentales ahora

yo le animo a que impulse esta serie de reformas reforma fiscal reducción

públicas y semipúblicas modificación del entramado institucional lucha contra el fraude fiscal reducción de gastos superfluo para que de esa forma liberando recursos pudiéramos disponer de más recursos para incentivar la actividad económica y crear

alternativa a cuadrar las cuentas y hay alternativa a los recortes de todo tipo que están presentados en este proyecto de presupuestos gracias

lehendakariak dauka hitza señor maneiro a mí no me gusta caer
permanentemente en los tópicos y a pesar de que hablar de realismo suponga o pueda parecer una interpretación de dramatismo

las medidas con absoluto realismo y con vocación de futuro de un futuro mejor porque tenemos claro también que estamos en un año inicial de legislatura y que nuestra proyección es para toda la legislatura me plantea nuevas medidas de futuro las tenemos y usted las conoce señor maneiro y aquí hemos hablado de las cosas que usted

de lo que es el redimensionamiento del sector público de fiscalidad dispone usted de una medida básica como es la propuesta de reforma fiscal señor maneiro

la propuesta de reforma fiscal una medida que el partido nacionalista vasco al que represento una medida que el partido nacionalista vasco ha propuesto a todos los grupos de esta cámara y usted la conoce señor maneiro con el objetivo de una fiscalidad

una medida que esperamos pueda contar con su respaldo este lunes señor maneiro vamos a presentar un plan de empleo un plan de empleo del gobierno vasco una medida social que se propone o que propone aunar esfuerzos para mantener los niveles de empleo y generar nuevas oportunidades una medida también que esperamos pueda contar con su respaldo

para los profesionales una medida para resolver una necesidad fundamental de la economía productiva y una medida que esperamos que pueda contar con su respaldo y tenemos también usted tiene la medida de las medidas es el proyecto de presupuesto

de resistencia de contención de este año y espero que pueda contar con su apoyo también señor maneiro eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa

muchas gracias señor lehendakari el otro día tuvimos conocimiento de la sentencia de la sala segunda del tribunal general de la unión europea sentencia de veintiséis de febrero pasado

definitivamente perdíamos una serie de fondos una serie de millónes de euros

noventa y nueve según el tribunal el porcentaje de gastos irregulares señalados entre comillas pongo pueden considerarse acertadamente sistemáticas y relevadotas insuficiencia sistémica en la gestión en los controles o en la auditoría de los contratos efectuados por el gobierno vasco ya que representan el veintiséis por ciento de los casos planteados que afectaban al treinta y seis por ciento de las cuantías

irregularidades sistémicas del gobierno vasco a la hora de adjudicar esos contratos según el tribunal pues son

principalmente infracciones de la normativa de la unión europea en materia de contratación pública tales como la modificación de contratos iniciales o la adjudicación directa de obras

complementarias y cuando uno empieza a leer estas cosas dice

los informes del tribunal vasco de cuentas dicen exactamente las mismas cosas

ya se lo autodevolvió la propia comisión en ejercicios posteriores

sabemos que evidentemente a partir de ahora en europa nos mirarán con más lupa que antes de una resolución como esta pero tampoco es

porque lo grave que es grave que hayamos perdido ese dinero en su momento puede ser grave que podamos seguir perdiendo dinero a futuro lo grave es que este gobierno vasco no digo el suyo que acaba de empezar sino los

digamos que no han tenido una especial sensibilidad en hacerle caso al tribunal vasco de cuentas a la hora de efectuar las contrataciones públicas

por revisar los tres últimos informes del tribunal vasco de cuentas dos párrafos

cuando todo sistemáticamente en el del dos mil ocho nos dice en cuatro contratos de obras se han producido modificados

que han supuesto incrementos acumulados del cincuenta y siete cincuenta setenta y seis y cuarenta y cuatro por ciento incumpliendo los principios licitatorios y luego viene el consejo de gobierno ha convalidado de acuerdo al procedimiento excepcional

de euros de contratos que evidentemente habían sido informados negativamente por la oficina de control económico

motivos por los cuales tenían el informe negativo

no observar los principios de publicidad concurrencia continuar prestando el servicio una vez

este es el del dos mil ocho nos vamos al del dos mil nueve y lo que cambian son las cuantías pero las frases son las mismas nos vamos al del dos mil diez

asciende a veintitrés coma ocho millónes de euros los que ha convalidado exactamente por los mismos motivos

que es el comienzo de legislatura nosotros suponemos que si le hacemos la interpelación como la hemos hecho este gobierno como todos los anteriores nos

nosotros sí vamos a intentar que estas cosas no ocurran y nosotros vamos a hacer lo que no han hecho los anteriores

por lo menos planteaban que año a año íbamos mejorando e íbamos a hacer las cosas y por eso nosotros aprovechando que estamos al inicio de legislatura aprovechando que todavía usted no tienen mucho dinero para poder hacer muchos contratos y entonces va a estar más limitado

es que este nuevo gobierno ponga los mecanismos necesarios para que estas cosas que llevan ocurriendo desde hace ya muchos años

era saber si este gobierno tiene intención en relación a los fondos europeos

todos los mecanismos legales de contratación pública que están

y porque las administraciones puedan tener las mejores ofertas y elegirlas es por lo que le hacemos esta interpelación es decir si este gobierno tiene previsto establecer algún mecanismo más además de buenas palabras de que esta vez sí se va a cumplir

en el inicio de esta explicación por lo tanto me va a permitir señor damborenea una precisión importante

no estamos hablando de un pago por sanción no se trata de un pago por sanción sino de una aminoración de la ayuda máxima concedida por los fondos estructurales

distinto el contexto de la interpelación que usted plantea hoy nos sitúa en los años mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y nueve en aquel momento gracias a la labor del conjunto de las instituciones públicas el denominado programa operativo país vasco mil novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y nueve

finalmente la comisión europea no permitió al conjunto de las instituciones públicas solicitantes disponer de parte de estos fondos

de la cifra de veintisiete millónes de euros que usted menciona señor damborenea usted es perfectamente conocedor de que la gestión de los programas feder

muy compleja diría yo es una gestión que está influida por tres niveles de normativa la normativa europea la normativa estatal

derivada de la confluencia de diversas normas reguladoras promulgadas por diferentes niveles de gobierno está en la base de la explicación de lo acontecido y lógicamente como expondré más adelante está también en la base de las decisiones adoptadas para que no vuelva a suceder

que fueron también auditadas esto es la comunidad valenciana y la comunidad andaluza las tres comunidades fueron auditadas y en las tres el resultado fue el mismo

de que el cruce de normativas diferenciadas al que he hecho referencia

que no ha sido otro que la aminoración que no sanción que la aminoración de la ayuda comunitaria inicialmente prevista el caso específico que nos ocupa es el de la ampliación o el de la modificación de determinados contratos de obra pública los procedimientos en ese período recuerdo

estaban amparados por la normativa de contratación estatal y estos procedimientos son los que no fueron admitidos por la comisión europea

y no fueron admitidos por la comisión europea al entender que no son acordes con el espíritu de las directivas comunitarias en esta materia

es que en los casos de ampliación o contratos modificados de los referidos contratos deberían haberse producido nuevos concursos pero volvemos otra vez a la disquisición en el amparo de la normativa estatal

de un mal uso de los recursos sino de diferencias de interpretación por eso la administración general del estado a través de la abogacía del estado

un recurso conjunto en nombre de las tres comunidades autónomas contra la decisión adoptada por la comisión europea y por la misma razón

está en el momento actual presente estudiando la posibilidad de interponer

conjunto a la sentencia emitida hace tres semanas como usted recordaba el pasado día veintiséis de febrero

no estamos sobrados de ingresos de ningún tipo y el gobierno vasco no lo está y menos aún podemos permitirnos perderlos en su caso por una gestión inadecuada tiene usted razón ahora bien la aminoración de ingresos no afecta a nuestra situación actual

y es importante conocer que la unión europea se reserva habitualmente el cinco por ciento de las contribuciones máximas concedidas hasta el momento del cierre definitivo de los programas fueron básicamente fondos provenientes de ese cinco por ciento

me plantea usted cuáles son las intenciones del gobierno vasco en relación a la necesaria adecuación a las exigencias de bruselas

en primer lugar respaldamos plenamente el recurso presentado por la abogacía del estado y somos además partidarios de plantear un nuevo recurso conjunto por parte de la abogacía del estado y de forma complementaria señor damborenea

la adecuación del gobierno vasco a las exigencias de bruselas va a ser

muchas gracias sí yo ya sé que la sentencia afectaba también a valencia y a andalucía pero en fin a mí no me preocupa que ellos les aminoren sus ingresos a mí me preocupa lo que nos minoran a nosotros

es decir al final el hecho cierto es que veintiocho millónes de euros

precisamente porque la comisión entendió que esas irregularidades detectadas y luego ratificadas por la sala segunda del tribunal general que le han dado la razón a la comisión digamos que nos hemos quedado sin esos veintiocho millónes yo entiendo

y le he explicado al señor lehendakari algo que el señor lehendakari ya conoce porque ha estado sentado también en esta cámara durante unos cuantos años

tribunal vasco de cuentas que estas deficiencias que detecta el tribunal europeo las viene señalando

al propio gobierno vasco y tenemos un gobierno vasco que año tras año según el propio tribunal vasco de cuentas públicas

se incumplen los principios de publicidad de concurrencia etcétera etcétera es decir entonces a nosotros qué nos preocupa eso

me parece muy bien que ustedes piensen en recurrir la sentencia

pues bienvenido sea pero a nosotros nos preocupa el tema de las deficiencias en la contratación

porque es que esa práctica es mala para la propia gestión de la administración porque cuando se fijan unas normas de cómo la administración debe contratar

se fijan porque es lo mejor para la administración y para las propias empresas para la concurrencia de las empresas y por eso están esas normas y cuando esas normas se saltan

y no pasa nada y además cada año se llevan digamos al consejo de gobierno más millónes de euros en el último han sido casi veinticuatro millónes casi

de fondos europeos veinticuatro millónes de euros a convalidar por contrataciones como le decía antes por no observar principios de publicidad concurrencia

por fraccionar el contrato es decir por las cosas que el propio tribunal vasco de cuentas viene denunciando desde hace mucho tiempo a nosotros nos parece muy bien que este gobierno recurra junto con el gobierno de españa

venía a cuento en si este gobierno por primera vez

va a tomar alguna medida para que en la contratación administrativa del propio gobierno dejemos de ver aparecer en los informes del tribunal vasco de cuentas

esas deficiencias o ilegalidades que se detectan año a año

a toda la normativa europea y lo que estaríamos

y el tribunal vasco de cuentas no tuviera que sacarle los colores en el informe del año dos mil trece

planteado con claridad la posición del gobierno en mi intervención inicial a su interpelación en cualquier caso insisto me va a permitir

en la complejidad de la materia que tratamos y creo además que la gestión de los fondos europeos hoy

creo que es adecuada lo es por parte del gobierno vasco como lo es también creo por parte del resto de las administraciones públicas que actúan en nuestra comunidad y a las que también ha afectado esta aminoración del programa operativo de los años noventa y siete noventa y nueve me estoy refiriendo en concreto a las diputaciones forales de araba de bizkaia de gipuzkoa y me refiero también a las corporaciones locales

yo no quiero minimizar el problema que usted plantea señor damborenea pero creo que es justo insisto contextualizarlo porque la captación de fondos europeos no es un proceso

es un proceso que requiere de una gestión activa y eficaz ante el estado y ante la unión europea y es un proceso que se ha desarrollado de forma adecuada por el conjunto institucional vasco insisto en lo que se refiere al tema que estamos hablando y no estamos hablando de datos nuevos y prueba de ello es que ha permitido traer a nuestra comunidad del orden de tres mil seiscientos millónes de euros desde el año mil novecientos ochenta y seis desde entonces y en mayor medida ahora

de adaptación a las exigencias de bruselas y en el día a día surgen

a los diferentes requerimientos de los reglamentos europeos así como a su interpretación por parte de la comisión el gobierno vasco en todo caso se adapta y se adecua a estas nuevas situaciones todas las deficiencias

por los gestores de forma que en las siguientes certificaciones no se vuelvan a repetir señor damborenea quiero recordar también y el caso que nos ocupa es el mejor exponente de ello que el proceso de cierre de los programas operativos es largo

entre la comisión los estados y los gestores directos de los programas resolver y adecuar los procedimientos es una parte del trabajo diario en programas de gestión tan complejos como el que nos ocupa para finalizar señor damborenea quiero volver al contenido concreto de la presente interpelación he mencionado anteriormente y reitero que la mayoría de las disparidades planteadas por los servicios de la comisión se centran

más en concreto son discrepancias vinculadas a contratos

bien ha recordado es muy importante remarcar que todos los contratos modificados y complementarios analizados por los servicios de la comisión eran legales

que la regulación española no era acorde la regulación española no era acorde al espíritu de la directiva comunitaria y a partir de este momento

del ministerio de economía y hacienda abordó esta cuestión esta circular última estableció que a pesar de su legalidad y salvo excepciones los contratos modificados y complementarios no deben ser certificados a la comisión en el marco de los programas operativos

y por el fondo de cohesión desde entonces el gobierno vasco sigue lo establecido en la citada norma

a las exigencias de las autoridades comunitarias en este ámbito por lo tanto señor damborenea estos aspectos están integrados en los procesos de gestión de los fondos comunitarios que aplica hoy el gobierno vasco la adecuación

este gobierno mantendrá la vigilancia para que sea adecuada y sea actualizada siempre que resulte necesario eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias presidenta señor lehendakari le pregunto le interpelo por la situación económica la situación financiera

el ayuntamiento de bilbao el ayuntamiento de barakaldo y la cámara de comercio de bilbao en él se ofrece un punto de encuentro para desarrollar actividades comerciales industriales profesionales y de ocio con el afán de dar servicio

por parte de los agentes que así lo soliciten el tribunal vasco de cuentas públicas certificó la semana pasada la delicadísima situación

de barakaldo se conocían los problemas de la infraestructura

concretas de un agujero al que los auditores solo ven una solución que aumente la aportación de dinero público parece que esa sería la única solución en el corto plazo pero lo cierto es que ni así quedaría garantizada su viabilidad a corto plazo el informe del tribunal sobre la actividad del recinto entre dos mil ocho y dos mil once constata su asfixia financiera

el año que viene el pago de ciento cincuenta millónes de euros al vencer los plazos de dos créditos firmados la década pasada para afrontar la construcción de la feria

los máximos accionistas de la sociedad tendrán que poner sobre la mesa setenta y cinco millónes de euros

superior a los seiscientos millónes de euros una cantidad que la diputación foral de bizkaia y el gobierno

hasta el año dos mil veintisiete e invierten doce millónes anuales cada uno para afrontar el crédito contraído con el banco europeo de inversiones doscientos cincuenta millónes el problema es que quedaban pendientes otros dos créditos firmados con diferentes entidades financieras sin tocar

de golpe en dos mil cinco el consejo de administración pretendía sufragar los ciento cincuenta millónes extras con la venta de terrenos de la antigua feria de muestras de bilbao

un hotel compromisos que no se han materializado a la fecha del informe

con los beneficios que se suponía debía dar la feria pero lo cierto es que en sus nueve años de vida el recinto nunca ha logrado números positivos

es evidente que es urgente poner en marcha cuanto antes un plan de choque para frenar la sangría económica que rodea al bec el tribunal vasco de cuentas públicas añade un dato que a nosotros

interés lo que dice el tribunal vasco de cuentas públicas es que la ampliación del euskalduna

y el palacio de deportes de miribilla obras financiadas en parte por la diputación son un freno para la posible reflotación del recinto de barakaldo lo cierto es que la caja del bec parece estar prácticamente vacía

millónes de euros disponibles el tribunal vasco de cuentas públicas asegura que ya no hay efectivo para afrontar las obligaciones de los últimos meses de dos mil doce

ha quedado sin dirección su consejero delegado el señor josé miguel corres ha cambiado de trabajo el pasado día veintidós de febrero fue nombrado presidente de los parques tecnológicos de euskadi puesto que

el señor corres se mantiene como consejero delegado en funciones por lo tanto la pregunta es qué hacemos

ante esta situación y por eso le interpelamos al lehendakari para que nos explique las medidas que el gobierno vasco se plantea tomar ante la gravísima situación financiera

se trata de una infraestructura muy vinculada a la actividad económica la mala situación general le está afectando también negativamente y este no es un problema exclusivo del bilbao exhibition centre

se ha registrado un treinta y cinco por ciento de disminución de visitantes en todas las ferias del estado así como una disminución de facturación del veinticinco por ciento la sobreoferta de espacio que algún día habrá que analizarlos por qué esta dicha sobreoferta

ha puesto en una situación complicada a todo el sector usted sabe que la extraordinaria contracción de la economía que se está produciendo en los últimos ejercicios afecta decisivamente a la actividad ferial porque se traduce de forma inmediata reducciones de los presupuestos de asistencia a las exposiciones feriales ante esta situación también ante esta situación los ingresos del bilbao exhibition centre se han reducido de manera drástica

severas restricciones del gasto no obstante la caída de la actividad está superando todas las previsiones de tal forma que la situación y debemos reconocerlo así exige nuevas medidas de choque como usted plantea para garantizar la viabilidad y el equilibrio

somos conscientes insisto de la situación y estamos trabajando junto con la diputación foral de bizkaia para contribuir a superarla

lo ha hecho el anterior gobierno y nosotros vamos a reforzar si cabe esa colaboración

es una infraestructura entendemos que necesaria e importante

escaparate para apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas especialmente en sectores de actividad muy significativos para la economía vasca

habrían desaparecido ferias importantes para este país como la feria ferroforma que se celebra esta misma semana

se plantea a mi modo de ver de forma intencionada a veces

pero también deberíamos considerar el coste que supondría

no haber contado con este equipamiento tras el cierre de la antigua feria internacional de muestras de bilbao

indirecta e inducida que esto hubiera representado para la economía vasca simplemente señor maneiro para reforzar lo que es

tiene una asistencia media de más de uno millón de visitantes al año

el impacto económico en este periodo está evaluado en más de seiscientos millónes de euros y desde el año dos mil cuatro ha generado cien millónes de recaudación impositiva

impositiva por lo tanto desde el gobierno vasco defendemos esta infraestructura como esencial para el conjunto del tejido económico vasco

y vamos a seguir trabajando para adoptar nuevas medidas correctoras y nuevos planes para optimizar y rentabilizar esta infraestructura ahora bien es justo reconocer y así quiero subrayarlo hoy en tribuna que en los últimos años el bilbao exhibition centre ya ha venido aplicando medidas

de estructura y de costes variables sí señor maneiro a este respecto cabe recordar por ejemplo que en los últimos cuatro años se ha pasado de una plantilla

junto a ello la búsqueda de nuevas actividades que redunden en una mayor ocupación del espacio ferial y también la puesta en valor

gracias señor lehendakari otra vez los lamentos otra vez la narrativa situación complicada la describe usted lo sabemos dice usted ustedes lo saben

qué es lo que se ha hecho hasta ahora esta es la pregunta y obviamente hay otra qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora qué es lo que van a hacer ustedes a partir de ahora además de describirnos la situación en la que se encuentra

plantean cuándo se van a poner en marcha

de nuevos planes de un plan de choque cuándo se va a poner en marcha todo esto creo que ya andamos tarde

datos de los últimos ejercicios yo efectivamente no tengo datos de los que hubiera representado el bec o de los que hubiera representado para euskadi

no lo sé no sé en qué situación nos encontraríamos ahora no sé si ha sido tan indispensable como usted lo ha descrito no lo sé no tengo datos usted

que ha representado más de cien millónes de euros de ingresos vía fiscalidad yo no tengo esos datos yo conozco la situación actual en la que se encuentra que es una situación

de una gestión absolutamente irresponsable durante todos estos años y una falta de control absoluta por parte de las administraciones lo cierto es que desde la diputación de bizkaia parece ser que están a la espera de que el gobierno vasco

director para que ponga en marcha el plan de choque que logre revitalizar esta infraestructura cuándo se van a dar estos pasos porque al parecer ya se acordó

a día de hoy no sabemos nada por lo tanto hay que poner también encima de la mesa

nefasta gestión llevada a cabo durante todos estos años y la falta de control por parte de las administraciones por cierto un dato más respecto a la contratación

destaca otra vez el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en diversos contratos de suministros y servicios así como en la adquisición de inmovilizado otra vez irregularidades lo cierto es que señor lehendakari

el cincuenta y cuatro por ciento sin embargo los gastos lo hacen solo el veintisiete por ciento

disminuye solo el once por ciento y esto en el último año porque en los años anteriores incrementó esto da cuenta efectivamente de la nefasta gestión que se ha llevado a cabo lo cierto es que en cualquier empresa ante un fuerte descenso de ventas lo que se hace inmediatamente es ajustar los gastos en este caso

aquí no hay problema con los gastos y lo que se espera es que luego llegue el dinero público para salvar la situación pero lo cierto es que no se han reducido los gastos como se tenían que haber reducido y los ingresos de explotación han disminuido en muchísima

por lo tanto esto es reflejo de una malísima gestión y de que sus responsables no pagarán las consecuencias lo cierto es que su consejero delegado se va a otro lado a trabajar y por tanto no asume la responsabilidad de esta nefasta gestión para terminar además de pedirle como pediremos en la moción correspondiente a esta interpelación de un plan de choque y de medidas concretas y de asunción de responsabilidades por parte de los gestores

se le de todo lo que pide no puede ser

no hay dinero para todo y la situación económica lo está demostrando no puede ser que todo lo que se pida por parte del diputado

se le dé y luego seamos los ciudadanos vascos los que tengamos que pagar esos desvaríos absolutamente fundamentales para nosotros no puede ser hay que hacer un uso más riguroso de los dineros públicos

la situación económica lo está poniendo de manifiesto y por lo tanto deberán asumir sus responsabilidades los gestores y las administraciones que han llevado

señor maneiro no le voy a seguir el juego de las descalificaciones y menos

entre territorios que puede servir para titulares en determinados medios de comunicación la verdad es que

en cuanto a lamentos y narrativa y usted ha hecho aquí una exposición también en base a una narrativa sobre lo pasado tampoco le entiendo muy bien cuando dice que no tiene datos y sin embargo

y además exigir responsabilidades sí lo ha hecho usted aquí en tribuna señor maneiro pide usted un plan de choque para frenar la sangría económica

y pide actuaciones urgentes para reorientar la actividad del bec estamos de acuerdo

precisamente se procederá en breve y usted lo ha planteado a constituir una nueva dirección y un nuevo consejo que serán los responsables de llevar el timón del

lo he dicho en mi primera intervención que existe ya un plan de choque para potenciar la actividad del bilbao exhibition centre y buscar el equilibrio operativo en su gestión es un plan realizado por el propio bilbao exhibition centre en noviembre del pasado año

para que lo analicen para que lo mejoren para que lo adecuen para ajustarse a la nueva situación y actuar con rapidez le puedo asegurar que el gobierno vasco pondrá y no es lamento no y está poniendo ya especial interés en este objetivo

contempla dos ejes de actuación señor maneiro por un lado apuesta por implantar un nuevo modelo de negocio y por otro lado y de forma complementaria contempla un plan de choque en el más corto plazo para reducir las pérdidas operativas del bilbao exhibition centre

en tres programas de actuación uno poner en valor todo el espacio disponible impulsando el alquiler para obtener fondos complementarios dos

adecuarlos a las nuevas necesidades y actividades y tres reducir los costes operativos sobre estos tres pilares el objetivo es seguir reduciendo los costes operativos más en concreto

uno coma tres millónes año de forma que se pueda hasta alcanzar el equilibrio operativo en dos mil dieciséis para finalizar señor maneiro reitero el interés estratégico del gobierno vasco en trabajar estrechamente con la diputación foral de bizkaia y con el resto de socios del bilbao exhibition centre para consolidar para reorientar y potenciar una infraestructura para el desarrollo empresarial y la internacionalización

del conjunto de la economía vasca estoy convencido de que si hoy la economía vasca exporta al cuarenta por ciento de lo que produce es en parte gracias también

las empresas vascas deben salir al exterior lo están haciendo y este gobierno impulsará que lo sigan haciendo con mayor intensidad

debe ofrecer espacios para que nuestros posibles compradores en el exterior conozcan nuestras empresas así como sus productos y sus servicios y en esta labor el bilbao exhibition centre es nuestro principal referente

señor lehendakari la semana pasada el representante de la republica islámica de irán un régimen teocrático dictatorial y represivo en el que se violan diariamente los derechos humanos

sorprendentemente recibido con honores primero por la mañana en este parlamento lo recibió la presidenta

fue recibido por la tarde en ajuria enea este hecho causó estupor indignación

numerosos colectivos sensibilizados y comprometidos con la defensa de los derechos humanos

su actitud le quiero preguntar cree usted que mereció la pena cree usted que hay algún motivo que justifique semejante error político y diplomático cree usted que hay algún motivo que justifique semejante renuncia a los principios democráticos que usted debe defender como representante de la sociedad vasca

eta diplomazia elkarrizketa da señor oyarzabal es muy sencillo españa tiene un embajador de irán porque el gobierno de españa mantiene relaciones normalizadas con irán

la seguridad que tiene uno de los peores registros en materia de derechos humanos

a su partido no al mío en cualquier caso concédame cuando menos como lehendakari el beneficio de la duda de que el lehendakari

señor lehendakari el rey efectivamente

en el desempeño ordinario de sus funciones porque es la constitución la que le obliga a hacerlo porque lo debe hacer para que irán pueda acreditar así

porque es su obligación que no la suya porque usted no tiene competencias ni obligación de hacerlo ellos sí pero es que a diferencia del ministro usted señor urkullu ni hizo hincapié ni mostró

por lo que está ocurriendo en irán ni usted mostró públicamente su preocupación por la vulneración de los derechos humanos

no sé si lo hizo en privado con él pero estas cosas hay que hacerlas en público porque usted no montó esta reunión

para hacerse una foto con él una foto que a mí me parece que es una foto de la vergüenza a mí me dolió personalmente y cuando vi esta foto con usted dándole la mano al embajador o esta otra de la presidenta ella no le daba la mano e iba vestida de negro no por protocolo sino porque es mujer y no le puede tocar

de irán no quiere y a mí al ver estas fotos no se me olvidan las imágenes de homosexuales ahorcados y colgados en las grúas de irán

no estamos hablando de un régimen normal con el que españa mantiene

estamos hablando de una dictadura que practica violaciones sistemáticas de los derechos humanos y usted lo sabe cientos de ejecuciones sin juicio cada año lapidaciones detenciones arbitrarias torturas persecución de las mujeres

pero es que es un país que se encuentra sancionado por la onu cómo puede hablar usted ese día que esa reunión tenía carácter económico

existe prohibición de comercio internacional con irán españa dejó de comprar petróleo en febrero de dos mil doce la unión europea en julio hay una prohibición embargo económico y diplomático de la unión europea y de la onu desde hace meses que españa está cumpliendo y que la unión europea ha pedido a todos un apoyo escrupuloso para hacerlo cumplir a mí me parece que desde luego no hay nada que lo justifique me parece que esa foto creo que no hay ningún motivo que la justifique creo que usted se equivocó

que usted tiene la obligación de no rebajar la exigencia con aquellos que vulneran los derechos humanos y era una buena oportunidad de hacerlo ese día creo que usted no puede contravenir tampoco los acuerdos internacionales y desde luego creo que es un error

usted utiliza para de alguna manera disculpar a don juan carlos primero

no reconocer o incluso puede llamar a consultas al embajador de irán

bien señor oyarzabal volvamos a la raíz de la cuestión no plantee usted unos principios aquí y justamente los contrarios cuatrocientos kilómetros al sur su gobierno autoriza

embajador y este gobierno autorizado por su gobierno visita euskadi mantiene una serie de reuniones con empresas vascas solicita una reunión al lehendakari

y le escucha sobre las cuestiones solicitadas por el embajador cuestiones económicas y el lehendakari también le habló señor oyarzabal también le habló

en presencia de la consejera de desarrollo económico y competitividad así como de la secretaria general de acción exterior y le hablé no solo de cuestiones económicas le puedo asegurar que le hablé al embajador de la cultura de libertad y democracia de nuestro pueblo simbolizada por el árbol de gernika le hablé de la cultura de respeto a todos los derechos humanos le hablé también

la legislación europea y le trasladé también nuestra preocupación por las sanciones que determinadas empresas pueden sufrir hablé

solo le pido coherencia no ya solo a usted sino al partido popular no exijan a los demás lo que no se exigen a ustedes mismos no defienda una cosa y su contraria

y esa carretera tiene las dos direcciones ambas direcciones si plantean ustedes allí lo mismo que aquí podremos entendernos si plantean ustedes allí lo contrario que aquí no podremos hacerlo

lo lamento lehendakari el otro día le hice la pregunta me contestó un consejero muy bien por cierto

contestarme usted da por respondida la pregunta al menos en la instancia inicial pero es que no es la misma pregunta que ha hecho el señor isasi la mía pregunta

la alternativa que usted plantea para el fondo en principio que se iba a nutrir

luego supongo que es que quiere reservar todo su tiempo para explicarse bien después

mire al señor isasi le ha dicho esta mañana que usted ponía el foco en lo importante

pero no todo lo que se publica es mentira generalmente no

dijo formalmente que se iba a constituir un fondo para financiar a las pymes con capital de las entidades de previsión social voluntaria eso es así y eso es lo que en el plazo de tres meses al que se había comprometido no va a usted a hacer y no no lo va a hacer y no lo va a hacer

es decir no lo va a hacer porque tiene la oposición de los sindicatos que tienen el cincuenta por ciento de los votos para tomar esa decisión en las epsv porque

invertir ese dinero que es para los complementos de pensiones en fondos que sean líquidos

nada más y claro un gobierno no puede

con las pensiones de los trabajadores y ahí viene el segundo problema tiene que garantizar al cien por ciento y entonces es una ayuda de estado y en el borrador que tampoco es

estas dice expresamente que garantiza el buen fin de la operación completa entonces yo le pregunto ha hablado usted con bruselas tiene usted garantizado que eso no se va a interpretar como ayuda de estado porque si no no lo saque por favor lo digo

probablemente porque ha anunciado también y no creo que sea mentira en la prensa va

mediante avales cualquier procedimiento que saque tendrá alguna variante pero es algo que ya está en marcha no que se haya sacado la legislatura pasada

y entonces lo que puede estar ocurriendo es que ya sé que el protagonismo político es legítimo pero no se puede buscar a cualquier precio porque para hacer algo que ya está hecho que está en marcha o que es una variante de lo que está

hay dinero de sobra en el mercado ahora mismo para financiar publicítelo y póngalo en pista porque lo que ha hecho durante tres meses hasta el último momento es distraer los esfuerzos para tratar de hacer posible lo que confebask le había propuesto y usted públicamente había aceptado porque si no para cualquier otro procedimiento de financiación

lo hay firmado lo ha heredado usted en su gobierno para más de un programa recuerde usted que el año pasado

un programa de cuatrocientos millónes al sesenta por ciento garantizado que pone en pista

el criterio del gobierno siempre ha sido el mismo y es muy sencillo de explicar

primero la necesidad las pequeñas y medianas empresas las personas autónomas y los profesionales demandan financiación del circulante demandan financiación del circulante segundo la respuesta del gobierno hemos comprometido que en el primer trimestre de este año vamos a dar respuesta a esta demanda lo he dicho en la primera respuesta en mi intervención primera de esta mañana usted podrá verlo en los próximos días y si usted ha seguido

entiendo que debe darse por respondido nolanahi ere eskari bat daukagu

o me habla usted de fracasos me habla usted de lo que hizo el gobierno anterior me habla de lo que dicen confebask o los sindicatos me habla de emplazar al actual gobierno con todos los respetos palabras y palabras de terceros señor reyes

en todo caso no creo que haga usted bien al hablar de haber constatado el fracaso de mi plan no creo que haga bien lo dejo ahí la sociedad sin embargo nos pide hechos y no palabras yo le voy a hablar de hechos el hecho importante es que este próximo martes el consejo de gobierno aprobará un fondo de financiación para pequeñas y medianas empresas para autónomos y profesionales en respuesta a la demanda de financiación

el hecho es que este fondo es un compromiso que adquirimos para el primer trimestre de este año y que vamos a cumplir el hecho es que este fondo se va a abrir con una dotación inicial de un límite de seiscientos millónes de euros por el que hemos venido trabajando desde el departamento de hacienda y finanzas el departamento de desarrollo económico y competitividad y el departamento de empleo

y no porque ningún agente ajeno al gobierno vasco nos lo haya solicitado así no señor reyes el hecho es que las pequeñas y medianas empresas van a poder

estoy tratando de evitar mirar atrás sinceramente porque lo que necesitamos es mirar adelante ahora bien como usted insiste le diré una cosa no voy a juzgar lo que hizo el gobierno anterior para financiar a las pymes y autónomos no lo voy a juzgar lo que sí le puedo confirmar

la demanda está encima de la mesa del gobierno vasco desde el mismo día en que llegué por lo tanto o no se hizo lo suficientemente bien o no se hizo lo suficiente

fondo de financiación se pondrá en marcha en buenas condiciones con carácter de urgencia y con todas las garantías

no invalida ninguna de las otras vías posibles señor reyes no lo invalida y seguimos trabajando

y si la necesidad se mantiene buscaremos la forma de darle respuesta este es el criterio del gobierno tratar de dar solución a los problemas que se le plantean
y se nos ha planteado este problema señor reyes eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua

señor lehendakari qué criterios maneja el gobierno vasco para permanecer sin exigir la retirada

a pesar de que este parlamento se le exigiera hace apenas un mes

radicalmente en contra de la lomce radicalmente en contra

lo que sí le quiero insistir como lehendakari desde una actitud institucional es que estamos en este momento en el ejercicio del diálogo que permita que esta ley

y no tenga ninguna duda señora celaá de que si la voluntad negociadora no encontrara respuesta satisfactoria este gobierno será fiel cumplidor

respuesta con amabilidad pero con firmeza he de decirle sin ambages que la respuesta

está dando a la política educativa de rajoy es

extremadamente débil no está ni a la altura de la gravedad del envite ni está a la altura de la exigencia de la comunidad educativa vasca

a la altura de la exigencia de nuestra historia la percibimos como imperceptible es incoherente porque por un lado estar como usted lo ha hecho aquí absolutamente en contra de la política educativa de rajoy y por otro lado se inclina por abrir un dialogo bilateral pero señor lehendakari quién pudiera

tratando de negociar con la ola mire usted con quién vamos a negociar con quién nos ha echado escaleras

diciendo y dándonos con la puerta en las narices en la afirmación de su propio gobierno de qué vamos a negociar señor lehendakari si este es un proyecto que nace de una filosofía totalmente equivocada que lo contamina entero que liquida la igualdad de oportunidades que liquida

que concentra todo el poder en el centro

en el acto de mayor desconfianza hacia comunidades hacia profesionales hacia centros educativos y hacia familias qué vamos a negociar de un proyecto

ganar a los diferentes con las mayorías absolutas y que da exactamente en la misma medicina al buey que al león

por eso yo le digo señor lehendakari que no cabe negociación posible

porque la cuestión es lo suficientemente grave como para saber que este es un proyecto no solo malo para euskadi

y malo para madrid también que no nos hará progresar que predestina nuestros niños y niñas a destinos desde luego sociales

y por lo tanto yo le pido que aclare la línea que la delimite con firmeza porque hay toda una comunidad que le está esperando

y que afirme que rectifique que realmente con ese proyecto no vamos a ningún sitio

para mantener el trasunto fácil de negociación con aquellos señores señor lehendakari la educación de futuro es cemento de presente y no admite ningún tipo de rebaje por favor con firmeza yo le solicito que usted

y que desde luego recuperé firmeza suficiente para defender el sistema educativo vasco que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos y desde luego el grupo socialista

señora celaá reitero lo que he dicho en mi primera intervención

que lo apoya y por lo tanto no tengo ninguna duda de lo que

está comprometido en relación a lo que es el planteamiento de toda la comunidad educativa y de lo que ha sido el posicionamiento de este parlamento insisto

del compromiso del departamento y en ese sentido desde la consejera y los responsables del departamento se han manifestado en relación al proyecto

insisto en lo que es el esfuerzo que podamos estar haciendo ante un problema que no lo tenemos aquí y en relación a lo que usted decía de lo que es la educación

por lo tanto a un viaje en el tiempo al tiempo en el que en este país

y creo que usted fue responsable y yo algo conozco también de aquel pacto educativo un pacto que han mantenido todas las consejeras y consejeros de este gobierno

del actual gobierno por qué por que es sencillo porque es un pacto institucional y creo que ahí está la fortaleza en lo que ha nosotros responde

sobre ese pacto hemos avanzado señora celaá sobre ese pacto tenemos que seguir avanzando el problema creo que no lo tenemos aquí porque el pacto educativo aquí

está en madrid donde los gobiernos españoles los en plural los gobiernos españoles llevan treinta y cinco años

lo que los anteriores habían comenzado a construir el problema está allí no aquí me pregunta por el criterio del gobierno señora celaá y se lo voy a decir

el criterio aquí del gobierno vasco es seguir fortaleciendo el pacto educativo avanzando en las competencias propias seguir tejiendo alianzas institucionales políticas y profesionales seguir trabajando con la comunidad educativa que sabemos muy bien qué es lo que piensa y es lo mismo que piensa este gobierno vasco centrar

amabilidad usted se ha caracterizado hoy en un furor exigente pero esta película

el gobierno de españa del partido popular la que usted ha mostrado la película que querría ver y no veré es la de su furor exigente con el gobierno de españa que ha sido del partido socialista obrero español señora celaá no tenga ninguna duda

voy a ver si esta vez tengo más suerte y me responden a la pregunta porque la pregunta anterior

se retrasa biocruces ni cuánto va a costar eso así que ahora

voy a tener también suerte de que me responda usted estupendo muchas gracias porque los ciudadanos en general y los pensionistas en particular

tanto cuando estuvimos al frente del gobierno como ahora en la oposición

de los servicios públicos de rechazo a los recortes y en el caso que nos ocupa de oposición frontal al copago farmacéutico planteado por el gobierno de rajoy y estamos en contra del copago porque es una receta equivocada para salir de la crisis invade competencias de euskadi y sobre todo porque es injusto porque penaliza a los sectores más débiles de la sociedad y porque a la larga tiene un efecto contraproducente para la salud

con dificultades económicas pueden verse tentados de escatimar en la compra de medicamentos

y provocando que la enfermedad vaya a más y requiera después una intervención mucho más costosa así pues nos encontramos con una medida que en términos de salud

de sostenibilidad económica también entiendo que después del pronunciamiento del tribunal constitucional suspendiendo nuestro decreto de veintiséis de junio

el gobierno vasco no pueda ser insumiso pero no ser insumiso

no implica abandonar a su suerte a miles de ciudadanos por eso me gustaría saber si considera agotadas todas las vías jurídicas para no aplicar el copago en euskadi y si es así si están agotadas todas las vías jurídicas si va a buscar formulas de compensación al desembolso económico al que se van a ver obligados los colectivos más vulnerables

roncal andrea quiero reafirmar por lo tanto la postura contraria al copago por parte de este gobierno hemos mostrado nuestra disconformidad con esta decisión del gobierno español aquí y en el congreso de los diputados

que en la legislatura pasada se aprobó una proposición no de ley entre el partido socialista de euskadi y el grupo nacionalistas vascos

al tribunal constitucional los ataques a lo que era el sistema educativo y el sistema sanitario sabe del compromiso del gobierno vasco representado por el partido nacionalista vasco nuestro sistema sanitario

está basado en los principios de universalidad solidaridad equidad y calidad de los servicios hauek dira beraz roncal andrea gure printzipioak hauek dira

realmente haya una respuesta a mi pregunta porque

pero lo que le he preguntado ahora es efectivamente si usted continua contra el copago

el tema del copago si tiene usted prevista alguna fórmula de compensación mire usted es inexplicable que cuando en el resto de países de europa como es el caso de alemania se está retirando el copago aquí empecemos ahora en el peor momento de la crisis a aplicar una medida recortadora de derechos como es esta y

el autogobierno nos dota de herramientas y capacidades como mínimo para compensar a ciertos sectores especialmente afectados no nos gusta el copago pero

que deje exentos a los más desfavorecidos en este caso concreto a las rentas inferiores

pensionistas que tenemos en euskadi el setenta por ciento es decir

por eso le pedimos que articulen mecanismos para que los usuarios vean automáticamente compensado el copago

hay vías probadas en otras comunidades como establecer un acuerdo entre sanidad y políticas sociales para que este sea

señora roncal he querido hacerle referencia a la ley de ordenación sanitaria de euskadi aprobada en el año mil novecientos noventa y siete

porque creo que es suficiente esa referencia y quiero ser cauto en el momento presente sobre lo que tenga que ser la gestión pública de esta cuestión de este debate

fruto del autogobierno y del acuerdo de esta cámara nos ha permitido ofrecer un servicio sanitario ejemplar

que nadie se ha quedado sin asistencia sanitaria o sin medicamentos por falta de medios económicos creo que es suficiente decir con esto en estos momentos

estoy convencido de que vamos a llegar a los acuerdos para mantener este servicio público esencial universal y de calidad vamos a conseguir que nadie se quede sin un medicamento porque no disponga los medios para ello señora roncal vamos a conseguirlo solo le pido que seamos cautos

no planteó medidas de compensación para paliar el copago farmacéutico entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad señora roncal no las planteó y no las presupuestó

no caigamos en la demagogia fácil usted sabe que los colectivos más desfavorecidos van a quedar exentos del copago la cosa es exentos

usted sabe que hoy todavía no hay una sentencia firme del tribunal constitucional usted sabe qué significado tendría esa sentencia no caigamos en la demagogia y busquemosel acuerdo para consolidar lo que hemos conseguido garantizar durante todos estos años nos hemos pronunciado de manera reiterada sobre esta cuestión

y mi pregunta es sinceramente señora roncal ayuda en algo que sigamos trayendo al parlamento este tema a modo de debate público he pedido que seamos cautos

egin duzue y para ir terminando para euskal herria bildu necesitamos un sector público fuerte en cualquier coyuntura para asegurar los servicios básicos de la ciudadanía creando empleo digno y de calidad pero una coyuntura como la actual

lastrado por las deudas y con una falta de financiación que le ahoga el sector público tiene que ser el motor de la economía

de la economía que pongan a las personas en el centro de esas políticas y eso ustedes decir lo dicen pero no lo hacen porque la realidad es totalmente diferente

que en un momento donde se machaca a los trabajadores y trabajadoras del sector público

que ver sus condiciones laborales con la creación de esta crisis

empleo en el sector público a su vez una de las pocas partidas que suma y que incrementa

destrozando todo lo que hay a su paso eso sí y que a día de hoy no tiene un informe coste beneficio decente y que justifique el hacer

para nosotros y para nosotras eso es apostar por el cemento y no por las personas clarísimamente eso sigue siendo

a esta crisis eta euskal herria bilduk

egun on zuri ere maeztu jauna podría haber habido alternativas

de manera menos traumática pero no ha sido posible

nos obliga a tomar decisiones por desgracia urgentes y de forma inmediata hemos cumplido los objetivos marcados en el plan económico y financiero de reducir un cinco por ciento los gastos de personal

cualquiera podría pensar que son declaraciones de un ministro de merkel o de un ministro de rajoy o en última instancia en euskadi

no son declaraciones de un alcalde de bildu y aquí el portavoz de bildu me decía ustedes dicen una cosa y hacen la contraria

en la misma línea que hacen exactamente lo contrario de lo que los portavoces

lo contrario se dice una cosa y se hace la contraria pero no íbamos por ahí yo no voy a mezclar el medio ambiente con la política internacional con la estrategia financiera internacional la historia

la lucha por las conquistas sociales si hay que entrar entraremos también en ese tema usted me preguntaba por otro asunto y voy a responder para que luego no digan que no respondo beno zuk galdetzen didazu

pero junto al propósito de asegurar que la administración pública actúe en sintonía con la sociedad a la que sirve

en el mercado de trabajo la actitud que este gobierno que la representación de esta administración ha tenido ante la mesa general de la función pública ha respondido también a otros criterios más específicamente relacionados con el régimen de la función pública que paso a describir pero a este propósito al efecto de referirme a estos criterios que han inspirado la actuación de la representación del gobierno en la mesa general de la función pública

de precisiones que considero imprescindibles para acotar el terreno en el que nos movemos no es cierto en primer lugar y quiero dejar constancia clara de ello

concurriese a la mesa general de la función pública con una propuesta cerrada e innegociable como

se podrá decir que las propuestas formuladas desde la administración pública no eran del gusto de los sindicatos se podrá afirmar por supuesto que sí lo cual por otra parte tampoco resultaría extraño sobre todo si se tiene en cuenta que días antes incluso alguna semana antes de se reuniera por primera vez la mesa general de la función pública algunos de esos sindicatos estaban ya

planteando protestas y movilizaciones en cualquier caso no se puede afirmar de ninguna manera que las propuestas de la administración no fueran abiertas

lo eran segundo tampoco es cierto que la negociación

porque entre esas reuniones del día veintiuno y del día veintiocho tuvieron lugar cuando menos ocho contactos bilaterales dos con cada una de las centrales sindicales estos contratos bilaterales

más concretamente la posición de cada central sindical lejos de la vocación escenificadora que suele presidir la participación en la mesa general de la función pública y en fin

considero necesario también recordar en este momento que la negociación en absoluto

incorporó igualmente otros aspectos a mi juicio muy importantes en la vida de un trabajador relacionados por ejemplo con la conciliación de la vida laboral y familiar el teletrabajo el régimen de la incapacidad temporal los contratos

una propuesta por ejemplo que despertó el vivo interés de muchos de los representantes sindicales gai horiek guztiak ere

de mecanismos de reparto de empleo basados fundamentalmente en la combinación de la reducción del tiempo de trabajo la eliminación de las horas extraordinarias

va a cumplir esta ley señor erkoreka eta lege berdinak esaten du

las administraciones públicas vascas regularán las relaciones laborales del personal a su servicio sobre la base de los acuerdos alcanzados en el proceso de negociación con los agentes sociales

hasta un máximo de treinta y cinco horas semanales eta atal hau ere indarrean dago

que afirme rotunda pública abierta y paladinamente que va a incumplir

ez en esta cámara he descubierto en el tiempo que llevo que hay básicamente dos posiciones en torno a la actitud que las instituciones han de adoptar en relación con la aplicación de las normas básicas del estado hay quienes preconizan una aplicación inexorable

que ha de imponerse siempre necesariamente probablemente porque

tras la opinión de quienes defienden esta tesis se oculta la tesis de que

los poderes centrales del estado ocupan una posición de preeminencia de superioridad con respecto a las comunidades autónomas y los entes locales y por tanto que los poderes territoriales no pueden nunca bajo ningún concepto

pero después hay quien sostiene que la aplicación de una norma básica del estado aquí tiene que ser modulada

cuando es dictada por el pp no mejor no me lo han dicho a la cara aquí en relación con las bases del régimen local

bildu lo que sostiene es que las normas básicas del estado

hay que incumplirlas y cuando se trata de administraciones gobernadas por bildu hay que

yo creo señorías que recordarán ustedes el primer debate que tuvimos en esta cámara después de la investidura lógicamente que tenía que ver con el adelanto de la paga extra de los funcionarios este gobierno

con la paga extra de los funcionarios en fin la correspondiente al segundo semestre del año dos mil doce porque fue decisión del gobierno anterior primero dársela y después quitársela

nosotros cuando llegamos aquí esa cuestión estaba ya resuelta pero sí desde eh bildu nos lanzaron toda una teórica en relación a la conveniencia

procedían del gobierno de rajoy a través de normas básicas que se aplicaban inexorablemente toda una teórica pero durante aquel segundo semestre del año dos mil doce hubo instituciones gobernadas por bildu que fueron particularmente diligentes a la hora de aprobar esas normas básicas del estado

el de donosti la máxima institución municipal gobernada por bildu también acordó desde el principio y no liquidó a ninguno de los temporales que liquidaron su

ni una sola de las liquidaciones incluyó la paga extra ni una sola otras fueron más remolonas

el ayuntamiento de laudio esperó hasta diciembre pero al final en diciembre protestó pero cumplió